la citada convocatoria porque supone el despido inmediato de setenta y nueve trabajadores

han reconocido el derecho a ser contratados indefinidos no fijos del ente público porque supone la destrucción definitiva de treinta empleos públicos que se suman a los diez que desaparecieron el año pasado sin que se hayan analizado las necesidades reales de la radio pública vasca

de radio en euskadi porque somete al ente de radio televisión pública vasca a un proceso que no tiene ninguna seguridad jurídica y porque provoca el conflicto social en e i te be ya sé que cuando digo esto

porque la convocatoria está en marcha como ya he dicho el consejo de administración aprobó esta convocatoria

pero es hoy cuando la dirección de e i te be ha insertado en los medios de comunicación la convocatoria no la semana pasada

qué falta de respeto con este parlamento que tiene como misión controlar al ente público y que es quien nombra entre otras cosas la dirección general de e i te be

a conocer la opinión de esta cámara pero han forzado que sea hoy

que las bases de la convocatoria y toda la información aparecerá

en estos momentos no se encuentra activa o sea que todavía no tienen preparada las bases o por lo menos no tienen los medios para que los aspirantes pueden ir apuntándose qué bofetada a este parlamento

con los grupos políticos que apoyaron la convocatoria pública en el consejo de administración los consejeros nombrados a propuesta del pnv y eh bildu

a favor de la convocatoria pública de empleo y estos mismos grupos tienen una mayoría holgada

pensaban en la dirección de e i te be que este debate podía modificar alguna de las posiciones que tome nota quien corresponda los argumentos que voy a plantear aquí los hemos

concretamente en el consejo de administración de e i te be donde no se han atendido nuestros criterios de prudencia rigor y acuerdo con los trabajadores que nosotros hemos planteado

son hoy ya evidencias el conflicto social ha estallado las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras de eusko irratia llevan días produciéndose

de las legítimas reivindicaciones laborales de cualquier empresa por eso no nos colgamos pegatinas

pero sí consideramos que este es el órgano competente donde fijar los criterios que deben garantizar el servicio público de radio televisión criterios que se están rompiendo por la puerta de atrás con información opaca y decisiones político sindicales en las que algunos se remiten a ciertos acuerdos que son desconocidos públicamente

creo que es conveniente que recordemos los hechos que han desencadenado esta situación el e i te be se produjo una situación laboral irregular y generalizada porque el entonces

se negó a asumir el límite que este mismo parlamento había establecido para su plantilla este parlamento

estructural y la dirección del señor ortuzar decidió saltársela

mediante la generalización de contratos mercantiles para cubrir plazas estructurales

de transparencia objetividad méritos y libre concurrencia en dos mil nueve una inspección de trabajo el fraude de ley de estos contratos los tribunales y las resoluciones de la propia inspección decretaron que se corrigiera esa ilegalidad con garantía de los derechos de los trabajadores

se produjo una explosión de los medios de comunicación de todo tipo explosión que se reflejó en la aparición de nuevas empresas de nuevas productoras

programas de televisión y también en el incremento de sus trabajadores y el pinchazo de todo aquello lo han sufrido muchísimos profesionales de la información que han padecido los despidos como solo el sector inmobiliario lo ha sufrido y que padecen aún las consecuencias de una precariedad laboral como también hemos dicho por unanimidad en este parlamento en más de una ocasión afecta también

de los profesionales para informar como corresponde

es ese el contexto en el que el director general señor ortuzar decide contratar por esa vía irregular eran exigencias del mercado se decía

e i te be también entró en el juego como el juego no era limpio llegan las denuncias y las inspecciones

estas empezaron a ser frecuentes en prácticamente todos los medios audiovisuales tanto públicos como privados de ámbito local autonómico o estatal y esto hace que se destapen infinidad de irregularidades de diferente condición actúan tanto las inspecciones de trabajo como las de hacienda

se encuentran a partir de la firma de contratos mercantiles que en unos casos sirven para que personajes famosos del mundo de la comunicación

y en otros como el que nos ocupa para incrementar plantilla sin pasar por los procedimientos requeridos alguien se ha atrevido a decir

en dos mil nueve en eusko irratia había intencionalidad política una de dos o manía persecutoria o interés por mantener escondidas las irregularidades quién puede ver intencionalidad política en hacer legal lo que es ilegal únicamente quien se maneja bien en la ilegalidad después de diferentes pasos aquellas dirigencias iniciadas por la inspección de trabajo a eusko irratia nos lleva a resoluciones de la propia inspección

son contratados con carácter de indefinido no fijo para cubrir plazas de estructura la actual dirección

lo digo entre comillas el supuesto problema que se deduce de las resoluciones de la inspección de trabajo y de las sentencias de los tribunales y lo hace desde nuestro punto de vista

mezclando sostenibilidad ajustes presupuestarios avances hacia el bilingüismo homogeneización de plantillas todo ello con absoluta falta de rigor

de momento lo que queda claro es una cosa habrá setenta y nueve despedidos de eusko irratia que es cerca del veinticinco por ciento del total de la plantilla

se pronuncie sobre ello otra consecuencia nítida es que si se concluye la convocatoria en el ente público e i te be

que antes que estos se suman como he dicho antes a los diez que ya se perdieron en el año pasado y también queremos que sobre esto nos definamos sobre estos treinta

esta convocatoria habrá de menos en el ente público queremos que esta cámara diga con rotundidad que e i te be no solo es la radio tiene que adaptarse a todos los retos tecnológicos económicos y laborales definiendo lo que necesita determinando lo que tiene y adoptando las medidas adecuadas para contar con los recursos humanos

para cumplir con su misión queremos que se analice cada uno de los puestos cómo se desempeñan cómo se deben adaptar una valoración rigurosa de los puestos de trabajo necesidades de formación y derechos que amparan al titular de cada plaza

es hablar de esto no es lanzar brindis al sol como ustedes hacen en su enmienda porque esto no es un proceso para hacer indefinidos a los trabajadores en situación inestable eh bildu los setenta y nueve trabajadores afectados tienen reconocidos por los tribunales su situación indefinida por algo tan sencillo como que su relación laboral no tiene fin son plazas estructurales según los tribunales déjense de eufemismos

que en caso de consumarse llevará a un nuevo embrollo judicial que va a suponer nuevos costes por mucho que la dirección no nos haya querido contestar a las varias preguntas que hemos hecho en este sentido

que reclama la ampliación del empleo público que luce camisetas de toda empresa en conflicto

defendiendo a esos trabajadores defienda en este caso que

de una empresa pública puedan perder su empleo a cambio de crear un reducido número de puestos de trabajo recorte nítido de empleo inseguridad y conflictividad eso es lo que eh bildu

expresamente en el consejo de administración los representantes designados por la izquierda abertzale hablaron de acuerdos alcanzados con la dirección

tampoco sabemos a quiénes afecta a qué nos referimos cuando décimos que esta convocatoria de empleo público nos llevará a una situación de inseguridad jurídica pues básicamente a dos aspectos uno que los trabajadores que han de ser despedidos tienen unos derechos reconocidos que sin lugar a dudas defenderán

sobradas garantías de ganar lo que provocará una inseguridad

además como he dicho antes del consecuente coste para la empresa y la segunda razón es que esta convocatoria se hace sobre la base de un informe jurídico que no despeja si a ella le puede afectar la disposición

generales del estado que dice que no se pueden celebrar ofertas públicas de empleo y que si se celebran tiene que ser entre personas que tengan una relación preexistente de carácter

por todo ello pedimos de nuevo que la dirección desista de esta convocatoria en los términos que se ha planteado que haga el trabajo de analizar los puestos en el ente

que haga una propuesta a los trabajadores que la consensúen que la eleven al consejo y si lo consideran también a esta cámara porque lo que queremos es una radiotelevisión pública para todos y para todas

para los ciudadanos vascos que es el horizonte que no debemos perder besterik ez eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

sí gracias presidenta buenas tardes a todos la iniciativa del grupo socialista pretende básicamente criticar una decisión injusta de la dirección de e i te be el hecho es que se ha planificado una ope para despedir a varias

sin haberlo negociado con los propios trabajadores en nuestra opinión no puede valer solo del consejo de administración nosotros desde hace años venimos pidiendo un verdadero redimensionamiento del ente público de todo el ente que suponga su adelgazamiento

su redimensionamiento esto evidentemente no significa que vayamos a avalar los despidos que se van a producir fruto de la ope que propone ahora la dirección

respetando los cauces legales y explicándolo a la sociedad y evidentemente hay que evaluar cada uno de los puestos de trabajo y las funciones que cumplen tal como por cierto se propone expresamente desde la enmienda presentada por el grupo popular nosotros

para que e i te be tenga las cadenas y las emisoras realmente necesarias para que sea de verdad un servicio público y para que sea también sostenible

la pluralidad y la imparcialidad en toda la política general de e i te be en su programación y en su gestión y en esa línea iba nuestra moción presentada

con el grupo popular y que todos los demás partidos políticos rechazaron hemos vuelto a presentar la misma moción como enmienda a esta iniciativa de los socialistas

rigurosa y seria transparente previo estudio a fondo de la situación reducción de la estructura para que se pueda prestar realmente servicio público y garantía de que exista profesionalidad pluralidad imparcialidad e independencia y de ahí nuestra enmienda proponemos que este parlamento

a dar los pasos necesarios para proceder al redimensionamiento del ente público reduciendo su estructura a la necesaria para ser un verdadero servicio público para la sociedad vasca presidido por la profesionalidad el respeto a la pluralidad la independencia imparcialidad el gobierno y el equipo gestor de e i te be se plantea en esta enmienda comparecerán en la comisión de control antes de seis meses desde la aprobación de esta enmienda para explicar las medidas que adopten o que pretendan adoptar para reducir la estructura del ente dicho esto me parece

importantes o especialmente interesantes algunas de las propuestas que plantea el grupo socialista y el grupo popular en concreto

los puntos dos y tres de la iniciativa original y el punto número del grupo popular en concreto cuando el grupo socialista propone instar la dirección

siga los cauces legales comenzando con una evaluación realista de todos y cada uno de los puestos de trabajo la negociación con los trabajadores y la seguridad jurídica

o cuando se propone instar a la dirección de e i te be a no alimentar conflictos laborales y situaciones de inseguridad jurídica que puedan afectar a la prestación del servicio público

cuando se propone instar a la dirección de e i te be a que proceda a la evaluación de todos los puestos de trabajo del ente así como de las funciones realizadas
en cada uno de ellos por lo tanto esos puntos serían los que nosotros apoyaríamos con nuestro voto nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

a todos y antes de nada dar la bienvenida a los trabajadores de radio euskadi que están hoy aquí presentes yo creo que no voy a agotar el tiempo y no es que

sino porque creo que sobre este tema las cosas están muy claras y están dichas

con dos únicos votos en contra la de esta parlamentaria y el otro representante nombrado a propuesta del partido popular de convocar una oferta de empleo público esta oferta de empleo público fue justificada desde la dirección de e i te be

determinados contratos por la necesidad de ordenar la situación de determinados trabajadores que según la dirección no habían entrado cumpliendo los requisitos legalmente establecidos

no había estado sujeto a las condiciones de igualdad mérito y capacidad en cualquier caso hay que decir y dejarlo bien claro desde ahora que la entrada al ente no se hizo a dedo como vulgarmente se dice

sino que se pasaron las pruebas que en su día decidió la dirección porque hay que dejar claro que fueron los equipos directivos anteriores

porque fue responsabilidad de los equipos directivos anteriores las fórmulas de entrada al ente

lo que se quiere con esta oferta de empleo público es hacer pagar por decisiones en su caso incorrectas de equipos directivos anteriores a los trabajadores se les quiere hacer paganos de una situación que en ningún caso fue creada por ellos se quiere hacer recaer la responsabilidad de las consecuencias de aquellas decisiones de incorporación de plantilla al ente que en su día pudieron tomarse de forma inadecuada tal vez sí pero se quiere recaer como digo esa responsabilidad a los trabajadores son casi una centena los trabajadores que a lo largo de este tiempo han ido entrando en el ente e i te be

en una situación de falsa interinidad y digo falsa interinidad porque las labores desempeñadas no eran coyunturales sino estructurales

acabó con esa interinidad y regularizó su situación porque los trabajadores cuya situación ahora se quiere regularizar ya lo están

porque el trabajo que estaban realizando respondía a necesidades estructurales del ente pero esta oferta de empleo público va mucho más allá es la primera oferta de empleo que lejos de suponer la creación de empleo lo que trae la destrucción del mismo ya que esta ope

además de exigir un perfil lingüístico bajo la premisa de que el reto

y como se ha señalado desde algunos ámbitos no se sabe si esto es una exigencia de la sociedad o es un deseo político si tenemos en cuenta que la sociedad medida

y esta oferta de empleo público y hay que decirlo bien claro va a suponer que setenta y nueve personas que en este momento tienen una serie de derechos laborales una relación indefinida de trabajo con e i te be

esta oferta de empleo publico no es tal es encubierto es una reducción de plazas y si es necesaria una reducción de la plantilla de e i te be lo que desde el grupo popular décimos es que se diga claramente

que se diga claramente que se necesita menos plantilla en el ente e i te be y que no se circunscriba a estos trabajadores porque

de los recursos humanos que defina y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos humanos y a juicio de este grupo y así lo ponemos en nuestra enmienda puede ser necesario una valoración de todos los puestos de trabajo sí

sí pero en función de las necesidades informativas lingüísticas técnicas o de formación de todo el ente pero que se diga claramente

debemos preguntarnos si con la reducción de las plazas se puede hacer la misma radio que se hace ahora o si para cubrir determinadas franjas horarias recurrir a productoras o a un modelo de radio distinto

con menos programas en directo con programas grabados que se diga claramente y es lo que no se ha dicho esta oferta de empleo público ha creado un conflicto entre los trabajadores todos sabemos

nosotros ya pusimos de manifiesto cuando este asunto se sometió a debate y votación en la reunión del consejo de administración de e i te be

todas las dudas que este asunto nos generaba y por ello tal y como lo he dicho antes votamos en contra de la misma en este consejo y lo votamos por varias razones en primer lugar porque consideramos que estamos ante un ere encubierto

si la dirección estima que la plantilla de e i te be es excesiva debe plantearlo así debe hacerlo de cara no debe esconderse pero debe hacerlo además

de las funciones que desempeñan de las funciones realizadas por productoras externas de cuáles son las necesidades del ente y después de analizado y estudiado todo ello plantear en su caso cuantas plazas son necesarias para cubrir estas necesidades en segundo lugar votamos en contra porque dudábamos

interina sino que es indefinida con el ente

porque están cubriendo puestos y necesidades estructurales de hecho los trabajadores anunciaron la judicialización del asunto y mucho

que les van a dar la razón porque creo que tienen muchos

porque dudábamos que con la oferta de empleo publico no se estuviese vulnerando la ley de presupuestos generales del estado para dos mil catorce publicada en el boe el veintitrés de diciembre de dos mil trece la que se regula en las posibilidades de empleo público que se autorizan

y así se establece la imposibilidad de que las sociedades mercantiles públicas

salvo contrataciones iniciadas en ejercicios anteriores u obligadas por planes plurianuales en ejecución no creemos que nos encontremos en ninguno de los supuestos que permite sortear la prohibición por ello desde aquí quiero anunciar

para pedir su colaboración para que si lo ven pertinente y nosotros así se lo vamos a pedir puedan impugnar ante los tribunales esta oferta de empleo público porque consideramos que es contraria a la ley de presupuestos de generales del estado del dos mil catorce y de esta forma paralizar esta ope

pero ya se lo dije también que tenemos conceptos distintos de la rapidez y la efectividad donde se tenía que haber

y no es excusa que aunque hubieran ustedes votado no hubiera servido de nada porque a tenor de la correspondencia entre los votos afirmativos en ese consejo

ustedes lo plantean si según usted señor unzalu daba igual que se votase que no o que se abstuviese en esa reunión del consejo porque en cualquier caso la ope iba a ser aprobada

si visto los que allí lo aprobaron tampoco aquí iba a salir nosotros lo dijimos entonces

aunque hemos presentado una enmienda porque consideramos que los dos únicos puntos claves aquí son dos uno anular esta ope que votamos en contra de la ope allí y la vamos a volver a votar aquí y dos que si de verdad se quiere hacer un estudio de cuál es el personal necesario

que no se juegue con determinados derechos de los trabajadores que se diga claramente cuánta plantilla necesita esos son los dos únicos puntos que nosotros hemos puesto en nuestra enmienda pero en cualquier caso vamos a votar a favor de la suya

creemos que esos trabajadores son trabajadores indefinidos que tienen unos derechos y que les debemos conservar esos derechos y que esta ope lo que va a hacer es lejos de crear empleo reducirlo

con lo cual nosotros votaremos a favor de nuestra enmienda pero también a favor de su iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

esta proposición no de ley presentada por ustedes la tendremos que entender como eso de somos republicanos pero comprometidos con la corona

porque desde luego mayor contradicción mayor despropósito utziko didazu esaten

izan behar denaz bukatzeko señora llanos indefinido no fijo hasta cobertura de plaza y la existencia de esa figura responde a irregularidades

sino porque no se dieron en condiciones de igualdad y de una valoración posterior

carteles barricadas todo lo que haga falta en defensa del empleo pero en lo correspondiente al empleo público ante todo igualdad

nos parezca convenientes eso no lo ponemos nosotros en duda sin embargo y antes de entrar a lo que es el contenido de las propuestas que estamos manejando esta tarde sí quisiera trasladarle

que consideramos esta propuesta el reflejo de una actitud básicamente

tardía y que trata muy probablemente de limpiar alguna conciencia mala por actuaciones del pasado

porque la resolución de inspección de trabajo que ya podríamos hablar y de sus curiosidades y bueno a ver si me da tiempo

me pueden contar ustedes señores socialistas que estaban en el gobierno qué hicieron para regularizar esta situación por qué en los dos años y medio siguientes ustedes no procedieron a organizar

puede bajar aquí y explicarlo hay algunos miembros de ese grupo parlamentario que estaban en aquella época en el consejo de gobierno pueden explicarlo por qué no lo hicieron nos parece que fue una política como en el rugby patada y hacia delante

en segundo lugar todo este proceso de la convocatoria pública de empleo es un proceso sobre el que ustedes como todos pero ustedes también el partido socialista ha estado perfectamente informado con pelos

hasta el último detalle y lo único que ustedes han hecho ha sido presentar una proposición no de ley sobre los aspectos

desde ese punto de vista además llegamos a un acuerdo y no teníamos en ese sentido ningún tipo de problema la única propuesta en este parlamento visible para debate

y en ese sentido no tenemos problemas y luego efectivamente como se ha dicho aquí en el consejo de administración de e i te be que es donde se toma la decisión

deprisa y corriendo aquí a presentar una proposición no de ley insisto de manera oportunista tardía y tratando

porque ustedes qué hubiesen propuesto si la convocatoria pública de empleo hubiesen sido setenta y nueve hubiesen estado de acuerdo sí no

en qué quedamos yendo al contenido

socialista yo creo que hay un aspecto en el que también un aspecto yo creo que erróneo en el que incurre también la portavoz del partido popular y esto no es un ere y esto no es un ere porque un ere se practica sobre una plantilla que es

y los puestos sobre los que estamos hablando son indefinidos no fijos por lo tanto conceptual y prácticamente

señora llanos esto no se le puede llamar un ere eso en primer lugar en segundo lugar plantilla estructural el término

no es un término jurídico es un término insisto de gestión y no es un término jurídico y ha podido haber alguna jurisprudencia pero siempre a los casos presentados por vía judicial por lo tanto para ser

indefinido fijo de e i te be hace falta pasar

unas oposiciones donde concurran los criterios de mérito capacidad publicidad e igualdad pero esto de que no son fijos no lo digo yo

en el año dos mil diez nos lo transmitió así por escrito y por vía oral al consejo de administración pero también en este parlamento

les voy a leer y les voy a leer literal lo que decía el señor surio

no entrará ningún trabajador que no haya superado las ofertas públicas de empleo

bien otra me han preguntado también por la posibilidad de que determinados empleados entrasen en la plantilla estructural de e i te be

desde luego nosotros no lo prevemos no lo contemplamos en absoluto

hay que pasar por los méritos de concurso público de oposición por lo tanto esto no es un ere la plantilla estructural es un término de gestión no es un término jurídico son desgraciadamente o

son indefinidos no fijos se habla de la plantilla estructural como si nunca se hubiese hecho en e i te be en e i te be se han

pero es que eso es algo evolutivo algo vivo que va cambiando ustedes cuando definieron la plantilla estructural de radio televisión española qué pasó luego ustedes los socialistas incoaron un ere donde bueno prácticamente la mitad de la plantilla a la calle señora llanos valencia

por lo tanto la plantilla estructural es un concepto y es una realidad que se va determinando con el tiempo porque es algo absolutamente evolutivo y la explicación de las necesidades actuales al margen que puede haber otros documentos está en la memoria de la convocatoria pública de empleo

cuáles son las necesidades y analizando cuáles son las necesidades a una determinada conclusión en relación eh bilduk aurkeztu duen

cuando habla de la naturaleza singular que tiene el trabajo periodístico pues evidentemente una radiotelevisión pública no es una fábrica de tornillos y requiere una

muy frecuente y seguramente a pesar de que se han detectado determinadas anomalías en el último informe del tribunal vasco de cuentas es cierto que el número de sustituciones va a ser

por la propia naturaleza del trabajo beraz gu horrekin ez gaude ados gauza asko esateko denbora gutxi baina a la señora llanos

extraordinariamente confuso si tenemos en cuenta cuáles son los posicionamientos tradicionales

igual nos sorprenden como esta mañana con el tema de la central nuclear de garoña pero no creo insisto en que esto no es un ere y que indefinido no significa ser fijo ustedes el bulto

alineados con lo que piensa el señor maneiro y cuando

ustedes hablan de un ere puro y duro y bueno

evidentemente explicaré porque no lo voy a dejar sin explicar todo lo que fue la gestión y el origen

además de explicar por qué nosotros defendemos el criterio de sostenibilidad en contraposición y termino ya a lo que han hecho otros partidos políticos en la gestión por ejemplo de radio televisión española telemadrid valencia

bien ha preguntado algunos grupos a ver por qué traíamos aquí esta iniciativa y es muy sencillo primero como ha dicho el señor uribe etxebarria porque le hemos considerado oportuno no oportunista traerlo aquí y porque consideramos que es importante que este

se defina sobre una cuestión tan importante como es el despido de trabajadores públicos y la eliminación de contratos de puestos de trabajo públicos creemos que esta cámara tiene que pronunciarse sobre eso porque e i te be es un

al control de esta cámara por eso simple y llanamente

soy demócrata pero no condeno el terrorismo no sé qué contradicción será mayor la que usted me ha dicho o la que yo le he planteado pero además es que en este caso

contradicción nosotros creemos

lo que se ha hecho con esta convocatoria pública de empleo viene de atrás ya defectuosa y le voy a decir cuando

ya se empezaron a destruir empleos públicos nosotros estuvimos en contra porque considerábamos y seguimos considerando que afrontar

tiene que hacerse desde el conjunto no cogiendo por partes hoy cojo radio vitoria por qué se consideraba que era uno de los elementos débiles de la cadena ahora cogemos los indefinidos no fijos de eusko irratia por qué

débil de la cadena nosotros no nos oponemos y lo hemos dicho reiteradamente a que se analice el conjunto de necesidades que tiene e i te be el conjunto de competencias profesionales que se tienen que ejercer en e i te be y se apliquen

que tengan esas competencias eso es lo que todavía no se ha hecho a pesar del plan estratégico nosotros queremos que se haga de esa manera nosotros lo que no queremos es que se haga hoy aquí pico aquí mañana pico allí y voy dejando

y personas en la calle eso es lo que no queremos que se haga que se afronte el asunto en conjunto que vayamos a ver qué necesita e i te be

y cómo voy a aplicar las competencias a esas necesidades que tengo para desarrollar la función que tiene que tener como radio de televisión pública vasca y ahí no hay ninguna contradicción y ustedes

nosotros nos abstuvimos en el presupuesto de la comunidad autónoma lo cual no quiere decir que lo apoyamos nos abstuvimos aquí y nos abstuvimos en le consejo de administración de e i te be

de que quien ejerció entonces de portavoz en el consejo de administración por los consejeros propuestos por el partido socialista dejaron nítido y claro que

por eso nos abstuvimos por correspondencia y por coherencia con aquello ustedes votaron en contra del presupuesto de la comunidad autónoma y sin embargo votaron a favor

creo que de momento estamos dando bastantes más muestras de coherencia nosotros que ustedes por ejemplo

el señor uribe etxebarria decía que

cuántos contratados indefinidos no fijos hay en la administración vasca en la administración general y en las empresas públicas y por qué empezar por eusko irratia

la clave de bóveda de todo esto es eusko irratia eso

cuando todavía no hemos definido la plantilla de e i te be cuando todavía no sabemos lo que queremos

los que están al frente de esta empresa tenemos que empezar por ahí nosotros a lo que vamos es y por eso nos hemos opuesto a esta convocatoria pública de empleo he dicho

lo primero que hacemos es setenta y nueve personas despedidas treinta empleos públicos menos

inseguridad jurídica conflicto laboral y también reducir la competencia del servicio público que se está dando esas son las cinco razones por las que nosotros nos oponemos a esto entonces que hay que regularizar hablemos en conjunto de regularizar

hacer modificaciones hagamos las modificaciones pero no empecemos

que son los eslabones más débiles de la cadena porque estamos perjudicando a personas a personas con nombres y apellidos a personas que van a ver visto cómo se va a destruir su empleo nosotros lo que queremos es evitar es eso y sobre todo queremos evitar que eso no se haga con rigor y eso no se haga

desde el punto de vista de afrontar las cuestiones con

enfade señor unzalu que no solo se lo he dicho yo es que se lo han dicho otros grupos que usted no se opuso a la ope que no se opuso

que se abstuvieron que luego les pareció que no habían acertado la decisión y han traído aquí esta iniciativa nos parece muy bien que yo ya le digo

una propuesta alternativa con los dos puntos que nosotros estimamos que son los pertinentes le voy a votar la suya

aquí hay tres asuntos fundamentales uno es el tema del empleo público otro

esos son los tres temas ustedes los representantes de bildu

priman el euskera sobre la situación de los trabajadores

esas plazas estén perfiladas es lo fundamental

a ustedes se les puede achacar cualquier cosa menos claridad en algunos términos y en este tema

el euskera por encima de la situación laboral de esas personas es así ahora una cosa le quiero decir no se rasguen las vestiduras cuando en otros momentos estamos hablando de empleo público

y es así se ganará en perfil de euskera

pero se está perdiendo empleo público luego en otras ocasiones cuando ustedes hablan pérdida o no pérdida de empleo público esto a tenerlo en cuenta y luego está la situación de los trabajadores mire

no sé si soy refutada jurista o no los términos jurídicos son para los tribunales y usted puede decirme lo que quiera no sé si es un ere

es que determinadas personas que hasta este momento están trabajando se van a la calle

a la directora y si no pasan el examen se van a la calle y es así

porque las plazas que se convocan son menos de las que están

llámelo como quiera en término jurídico llámelo como quiera pero se van a la calle

y se lo he dicho los responsables de cómo entraron

por igualdad mérito y capacidad no son ellos y yo no sé si los términos de necesidades y plantillas estructurales que son términos jurídicos evidentemente y que se decidirán y que en un momento determinado la inspección de trabajo lo decidió pero se estaba haciendo de una manera irregular para conseguir cubrir puestos

de la radio se tenía a personas en una situación irregular de eventualidad y lo que viene a decir y eso sucede en muchas situaciones jurídicas

no es algo interino luego ya están regularizados

ustedes lo que quieren es perfilarlo y reducirlo porque mire sabe lo que le pasa al partido nacionalista vasco y lo que le pasa a este gobierno vasco

y guardar la ropa que quiere estar a las maduras pero nunca a las duras y gobernar es tomar decisiones y si es necesario llevar a cabo una reestructuración de plantilla como se han hecho en otras televisiones se hace pero se dice

y se dice no tengo no hay suficientes fondos públicos para mantener esta plantilla y se dice y se es valiente

y lo que no se puede hacer es lo que ustedes pretenden no voy a hacer una oferta de empleo público y encima parece que crean empleo que no que lo destruyen

no sé como entró pero como entró no fue su culpa y se mantuvo durante mucho tiempo durante mucho tiempo y no regularizaron la situación ni unos ni otros no la regularizaron

eso sí las nuevas plazas menos de las que existían y perfiladas con euskera eso sí pero esa gente en la calle esa gente en la calle

con el dinero que en este momento tienen las arcas públicas vascas con las necesidades de e i te be no hay que hacer un redimensionamiento de la plantilla

y en función de eso ver si hay o no hay necesidad de contratos con productoras si hay o no hay necesidad de toda la plantilla pero decirlo ser valiente lo que uno no puede hacer ya le he dicho es nadar y guardar la ropa

y encima disfrazarlo de una ope que no llámelo llámelo como quiera van a echar a gente a la calle y se van a quedar con menos plantilla de la que tenían antes y ustedes

el ejemplo de televisión española de la televisión no claro han tenido problemas y han tenido protestas y ustedes también

no son tontos los trabajadores saben perfectamente
lo que es esto y ustedes lo que están haciendo llanos andrea sí voy acabando señora presidenta

eta horregatik komentatu dizut komentatu dizudana señora llanos no es cuestión de valentía es cuestión de haberse leído los papeles usted se ha leído la memoria usted se ha leído lo que es la decisión del consejo de administración

evidentemente que lo sabemos pero cuál era la otra opción echar a setenta y nueve y no convocar ninguna convocatoria pública de empleo no

es una situación muy complicada muy difícil que nosotros evidentemente lo sabemos pero

estable de cara al futuro va a haber más empleo estable con esta convocatoria pública de empleo y

es una nueva teoría del partido popular no sé si el señor montoro la asumirá pero esto de que

no sé dígaselo cuando nosotros hablamos de madrid

es porque precisamente allí no se llevó a cabo una gestión de los entes es lo que queremos hacer y fíjese cuál ha sido el resultado y no voy a entrar en más detalles en valencia en madrid en radio televisión española porque no voy a tener tiempo en todo caso nosotros

lo que pretendemos señor unzalu otra vez palabras del director general anterior decía el señor surio en el año dos mil once

en concreto ha cambiado mucho el panorama redefinir

el modelo publico por los recortes ya no será nada como antes tenemos que intentar que no afecte a una televisión o radio televisión publica de calidad hay un profundo debate

y añadía en esa misma entrevista los gastos de estructura tampoco pueden crecer y se han convertido en un problema más

mercantiles y eso supone una hipoteca y decía también que estaba negociando

pues la realización o llevar a cabo una ope de donde viene todo esto esto viene del año dos mil tres por cierto

agerraldi bat egin zuen eta azaldu zuen en el año dos mil tres lo que se produce con el señor ortuzar

una nueva interpretación de los contratos de obra una interpretación mucho más dura mucho más restrictiva

enfrentarse a la situación y buscar una solución otros que pensamos que no han hecho había tres opciones

contratar servicios para radio en productoras en televisión sí es más habitual en radio no tanto o despedirlos sin más

fue contratar a todas esas personas bajo una contratación mercantil existían precedentes se buscó una solución

la dirección general de entonces a una nueva situación con consenso y dio muy buenos resultados y he hablado aquí más de una vez de la q de oro

y no me resisto a no leer lo que algunos grupos parlamentarios dijeron

quiero agradecer las explicaciones del señor ortuzar dijo la señora celaa tras su comparecencia aquí en el parlamento para

no hay cuestión quiero agradecer las explicaciones del director general que por otra parte ya conocíamos a través del consejo de administración eso

eta eskaini duzun informazioa ere eskaini duzun bezala nik eskertu egiten dut por lo tanto todas las instancias institucionales administrativas

el propio convenio colectivo tuvieron conocimiento de todo este tipo de operación y no hubo ningún problema durante cinco largos años las casualidades no me da tampoco mucho tiempo pero no me resisto tampoco a no decirlas las casualidades primera

surio en julio del año dos mil nueve y a los pocos días una inspección de trabajo

voluntad propia primera curiosidad segunda curiosidad al año se produce el dictamen de inspección de trabajo e inmediatamente después esa persona la que realizó la inspección fue elevada a la categoría de delegada del trabajo del gobierno vasco en bizkaia muchas casualidades
nosotros los que décimos es amaitzen jun uribe etxebarria jauna que nadie
en absoluto en cuestión esa regularización que se hizo

mercantiles absolutamente nadie y que todo esto lo que demuestra es

una política de sostenibilidad del ente afrontando los retos del día a día pero mirando al futuro porque es un ente y es un servicio multimedia

evolución y no es algo estático por tanto hay que saber adaptarse a las situaciones y es lo que está haciendo la actual dirección general eskerrik asko uribe etxebarria jauna

nola doaz sí pediría la votación por puntos por favor

de la iniciativa original bale lehenengoa eta hurrengo biak

garapenerako oinarriak direla la propia mesedez isiltasuna la propia

decía que el emprendimiento el aprendizaje como lo queramos llamar

pasa behar dela se trata de pasar en este tema de las palabras a los hechos

aprobó y se presentó primero mejor dicho el plan de apoyo a la actividad emprendedora

cumplimiento por fin y digo por fin al artículo trece de la ley de emprendedores porque la ley de emprendedores preveía que cada año se aprobara un plan en relación a los emprendedores este era el primer plan por lo tanto dos años de retraso el primer plan de apoyo al emprendimiento en euskadi esta ley está claramente incumplida

señalar y no se han desarrollado muchas de sus previsiones y en concreto la referida

con dos años de retraso ekintzaileei buruzko laguntzei buruz en relación a las ayudas al emprendizaje

a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales las dos en el marco de proyectos locales de emprendizaje con intervención de las entidades locales colaboradoras en el primero de ellos en el apoyo a las personas promotoras de nuevas ideas empresariales el importe

y las actuaciones se tenían que desarrollar con una duración mínima de tres meses

el plazo de presentación de las solicitudes para las entidades colaboradores diez días hábiles y el plazo de solicitud de las personas que querían acogerse a estas ayudas de cinco días estas

se han demorado y ha habido un retraso en el pago de las mismas en el pago de las ayudas previstas en esta primera convocatoria en relación a la segunda convocatoria ayudas dirigidas a impulsar la nueva marcha de actividades empresariales el importe es

para actuaciones llevadas a cabo durante tres meses antes del treinta de noviembre

colaboradoras para presentar sus proyectos diez días y las solicitudes

en cinco días sí es cierto que había el pago en dos plazos de esta subvención

por persona aquí también ha habido un retraso en el pago de estas ayudas reconocido por lanbide e incluso

la correspondiente disculpa a los afectados y se señalaba que había habido problemas

meses y meses de retraso creemos desde el grupo popular y cuando se presentó la iniciativa relativa a la primera convocatoria instábamos

a proceder a que el gobierno vasco a que lanbide concretamente procediera al pago inmediato de las cantidades pendientes recogidas en la resolución diecisiete de octubre dos mil trece qué casualidad

de estas ayudas correspondientes a la primera convocatoria a la que he hecho referencia unos días después de presentada la iniciativa del partido popular creemos que hay confusión en esta materia y una prueba palpable de ello se aprobaron dos resoluciones parecidas el mismo día para objetivos más o menos similares creemos por otra parte que los plazos previstos en las dos resoluciones en las dos convocatorias de estas ayudas se han concatenado claramente y han llevado también a que las entidades locales colaboradoras

solicitantes hayan tenido que andar deprisa y corriendo y luego los pagos del gobierno vasco se han retrasado ocasionando claramente un perjuicio con ello a los ciudadanos

ayudas para poner en marcha proyectos empresariales o ideas de montar un negocio que acarrean demasiados

más fácil y sobre todo haber sido más ágil a la hora de abonar estas ayudas ha habido un retraso evidente y vuelvo a repetir las entidades locales y los solicitantes han tenido que andar deprisa y corriendo viendo también los plazos

y luego el gobierno vasco no ha tenido prisa en pagar desde el partido popular hemos denunciado

la demora en el pago de estas ayudas también el plan local dirigido a las entidades locales

próximamente a raíz también de presentar la correspondiente iniciativa

correspondiente a dieciséis millónes de euros pero como decía desde el grupo popular queremos volver y aprovechando que está hoy el lehendakari presente en esta cámara

en este momento quiero decir que está aquí y tenemos la oportunidad

y compromiso con las políticas de empleo señor lehendakari porque

y el empleo mejor dicho el desempleo de las personas desempleadas en euskadi es la primera preocupación de los ciudadanos este es el primer problema de los ciudadanos vascos

a reclamarle una política global a medio plazo

porque vemos demasiada precipitación en este gobierno en relación a las políticas de empleo vemos que falta coordinación vemos que hay demasiadas políticas de corta y pega en los planes que se nos presentan vemos que se juntan plazos que concatenan retrasos cuando estas ayudas deberían ser absolutamente prioritarias

esperemos que como ya se ha procedido o se está cumpliendo el abono de las cantidades correspondientes a estas dos convocatorias se den celeridad en convocar las ayudas previstas

quiero agradecer a los grupos que van a apoyar

cuyos puntos van dirigidos expresamente a poner deberes a este gobierno en esta materia que desde luego es la primera preocupación de los ciudadanos vascos y en relación a las convocatorias

a que proceda a la convocatoria de las ayudas correspondientes a cargo del ejercicio dos mil catorce antes de finalizar el presente período de sesiones es decir no queremos más demora señor lehendakari queremos que las convocatorias

las veamos antes de finalizar este período de sesiones por otra parte como he hecho referencia a la concatenación de los plazos a que los plazos son muy justos el plazo para la homologación de las entidades colaboradoras estaba previsto en diez días el plazo para la presentación de las solicitudes

que querían acceder a estas ayudas cinco días en un segundo punto planteamos que el plazo tanto para la homologación de las entidades colaboradoras como para la presentación de las solicitudes sea de al menos treinta días creemos que es un plazo razonable y creemos que se puede tener obviamente en cuenta queremos también

sea más flexible que también atendiendo al proyecto concreto que se pueda presentar y queremos también que el gobierno vasco abone las ayudas en un plazo no superior al mes desde su aprobación y que no se produzcan los retrasos

como estamos viendo en el abono y en el pago de las ayudas previstas en estas convocatorias otro de los puntos que se recogen en este acuerdo es que

es decir que pueda haber una vinculación entre las ayudas y que se pueda dar cobertura también a todas las solicitudes y también finalmente que se tenga también a la hora de valorar las distintas solicitudes

creemos que es un acuerdo absolutamente necesaria dado la actitud

que saca convocatorias con ayudas concretas en este caso dirigidas a personas emprendedoras se nos llena la boca a todos de que es el motor de nuestra economía pero luego no pasamos a los hechos señor lehendakari y vemos que cuando hay que proceder al pago y al abono de las cantidades correspondientes hay un retraso

un retraso significativo que hemos denunciado la mayoría por no decir todos los grupos de la oposición de esta cámara y por lo tanto creo que es una buena oportunidad para ponerle deberes a este ejecutivo para que salgan las ayudas correspondientes al ejercicio dos mil catorce y para que no vuelvan a suceder el hecho de acontecimientos y de sucesos en relación con las convocatorias

den neurria da y esto también está ocurriendo decimos entendemos que es algo que va en contradicción con la difusión o con la intención o el objetivo de la sensibilización hacia la cultura emprendedora

se están dando casos en los que realmente hay personas emprendedoras que desde todos los puntos de vista desarrollan planes de negocio es decir los tres puntos de vista que tanto socialmente económicamente como financieramente son proyectos viables

en situación de desempleo pues no pueden optar a estas ayudas

entendemos que va un poco en esa contradicción y además

trabajando en cuenta ajena si dejan un trabajo para emprender su propio negocio

ya sabemos cómo están ahora las cosas pero de alguna forma puede crear otro puesto de trabajo

baino ez dira alboratu behar den eredua dela adierazteko centrándome en la enmienda transaccionada solicitaríamos

sí solicitaríamos como decía la votación por puntos en el primer punto votaríamos a favor por lo que

a que la siguiente convocatoria la publique ya y bueno pues con ese tema estamos de acuerdo en el punto dos nos abstendríamos también un poco

estas convocatorias tendrían que ser abiertas de cara a mayor

el tema del plazo sí es verdad que estos treinta días mejoran lo existente pero bueno nos sigue pareciendo

en ese punto nos abstendríamos respecto al punto tres

votaríamos a favor el punto cinco también y respecto al punto

de la esencia de nuestra enmienda he visto que ha habido también voluntad

por el otro grupo enmendante y agradecer también el incorporar esa parte de nuestra enmienda entonces bueno por supuesto que ese punto también votaríamos a favor eta momentuz ba hori

en efecto la parte prepositiva de esta iniciativa

a hacer el abono de estas ayudas fue resuelto pocos días más tarde lo cual vendría a plantear que la iniciativa quedaba digamos fuera de lugar o que resultaba extemporánea sin embargo yo le agradezco señora garrido que la haya mantenido porque esto nos permite desde luego debatir una vez más y las que haga falta sobre cómo se están llevando a cabo las políticas de empleo y qué desarrollo llevan

a que efectivamente se puedan cruzar acuerdos que permitan llevar a cabo lo que es la acción

efectivamente el diecisiete de octubre el director general de lanbide

una que iba para las acciones locales de promoción de empleo otra que iba para las actividades empresariales en el marco de proyectos locales de emprendizaje

personas promotoras de nuevas ideas empresariales debo reconocerles que estas tres convocatorias a mí me confundieron y yo presenté la enmienda entendiendo que era otra de las cosas

porque la portada o la presentación hablaba solamente

a mí me daba sin haber leído el resto me llevó a esa confusión en todo caso eso tampoco importa mucho porque de lo que vamos a hablar ahora aquí es efectivamente de lo que ha planteado la proponente

es verdad que el señor consejero en comisión reconoció el retraso cosa que le honra porque la franqueza yo creo que siempre es una virtud y

hace falta también un propósito de la enmienda y el propósito de la enmienda que hemos transaccionado efectivamente no es otro que el de urgir al gobierno a que estas políticas estas políticas en concreto y estos programas ahora ya nos ceñimos

tengan una mayor diligencia de manera que en lo que queda del periodo de sesiones perfectamente puede con cargo al ejercicio dos mil catorce llevarse a cabo las convocatorias y por el contrario ampliar el plazo

puedan acudir a las mismas con un poco más de tiempo con mayor reflexión en fin y sin la precipitación que parece ser se ha dado en algunos de los casos

por eso décimos las convocatorias del dos mil catorce háganse ya no vamos a esperar hasta octubre o noviembre porque es que entonces la realización de las mismas

no hay una correspondencia entre los ejercicios presupuestarios y las acciones de gobierno y entendemos que siendo como es además el empleo una de las prioridades yo creo que de todos los grupos políticos pero señaladamente del partido de gobierno que en su programa también nos decía de forma muy vehemente prioridad

hay también que demostrarla con una mayor diligencia y una mayor agilidad

y por lo tanto esto no es en modo alguno un reproche porque como digo el departamento y el consejero del ramo en su momento explicó que efectivamente sentía el retraso y de disculpaba por ello por lo tanto

en ese retraso que ha ocurrido efectivamente pero que nosotros entendemos que llevando a cabo ahora las convocatorias y ampliando los plazos

en la transacción a la que hemos llegado el grupo popular y nosotros decíamos ya se ha señalado también que bueno los plazos por ejemplo para las entidades colaboradoras era de diez días

ya preexisten y están llevando a cabo este tipo de actividades lo que pasa es que la documentación que se exige en estas convocatorias hay que prepararla y lo que nos dicen algunas de esas entidades es que les ha obligado a actuar con mucha precipitación por lo tanto entendemos que hay que abrir ese plazo que podría ser de treinta días o más es decir entendemos que hay que dar flexibilidad a todas estas cosas

no se vean digamos constreñidos u obligados a tenerque hacer las cosas con el pie forzado de plazos perentorios la

es que el plazo de tutorización sea flexible y en función del tipo de proyecto claro aquí se planteaban tiempos de tutorización de tres meses

para todas las ideas claro hay ideas que por su naturaleza o

la complicación que encierran en sí mismas pueden exigir un tiempo mayor de tutorización y otras ideas pueden ser mucho más simples no por eso igual

o realmente ocurrentes pero a lo mejor en su apoyo y tutorización no necesitan de un tiempo tan dilatado por eso planteamos que la tutorización no sea

taxativamente de tres meses sino que sea flexible en razón de que muchas de esas ideas que se plantean pueden tener diferente naturaleza y exigir

luego planteamos que el gobierno vasco realice el abono de esas ayudas en un plazo no superior a un mes desde su aprobación efectivamente

esta dilación en el número cinco planteamos otra cuestión no menor

que las partidas de ideas o de actividades queden vinculadas porque parece ser no tengo el dato fehaciente pero hasta donde he podido saber

que a la convocatoria de actividades que tenía una dotación de uno millón de euros

entonces si no se agotan las cuantías de uno de los programas que se incorpore a la otra eso es lo que entendemos que debe de ser

ambos programas es decir si hay una de las convocatorias que no requiere el destino de todos esos fondos

por último efectivamente pues también que se tenga en consideración que aquellas iniciativas o aquellas ideas o actividades que tengan una incidencia

en base a sus necesidades también sea tenida en cuenta hay más cuestiones que aquí no se han recogido para favorecer y facilitar el consenso pero que también habría que considerar por ejemplo una de las exigencias que hay en estas convocatorias es que los solicitantes nunca hayan estado

en el iae o como trabajadores autónomos claro eso es desconocer la naturaleza del emprendedor el emprendedor muchas de las veces es persona que ha tenido tentativas anteriores

una buena idea o que no tenga voluntad y afán de emprender pero este tipo de requisitos quedaría descalificado y por lo tanto entendemos que esa es también una de las cuestiones que habría que mejorar es decir mejorar o por lo menos suprimir en el sentido de que por qué una persona que haya estado

tiene una idea reúne todos los demás requisitos no puede emprender una iniciativa de ese tipo que podría ser plausible entendemos que eso es una limitación que no procede

mano de las entidades colaboradoras pero no se trata de reproducirlas aquí yo creo que el gobierno lo que debe de hacer para mejorar esas convocatorias para que haya una mayor coordinación con las mismas en todos estos planes lo que tiene que hacer es contrastar el parecer de las mismas y saber

el que haga aquí una reproducción de algunas de las

lanbide o el departamento de empleo con esas entidades colaboradoras y que conozca de primera mano cuáles son sus aportaciones para mejorar estas convocatorias y este

entendiendo que efectivamente la prioridad del empleo exige más que palabras acción acción y decisión

pretende dar cumplimiento a la convocatoria de ayudas acordada por lanbide y el día que presentó la iniciativa en el registro el día once de abril ya se había procedido

no enmendamos la iniciativa original las ayudas para impulsar nuevos proyectos empresariales por personas emprendedoras cuentan como ya se ha explicado con unos recursos económicos de uno millón de euros de los cuales quinientos mil corresponderán al presupuesto ordinario de dos mil trece y quinientos mil al presupuesto de compromiso para este año dos mil catorce

el abono de dichas ayudas se ha retrasado sí como han

otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra baina gaur egun dirulaguntzak ordainduta daude beraz gelditu gaitezen datu positiboekin

y nuevas actividades empresariales se apoya a trescientos diecisiete personas promotoras con un importe total

el viernes once de abril de dos mil catorce o el lunes

ajeno a la voluntad del gobierno se produce el pago de las entidades del importe total de la convocatoria de ideas según lo establecido en las condiciones de la misma

asimismo se abona el cincuenta por ciento de la convocatoria de actividades empresariales

para que como establece la convocatoria las entidades colaboradoras lo trasladen a las personas beneficiarias finales el cincuenta por ciento restante de las convocatorias de nuevas actividades empresariales se abonará

por parte de las beneficiarias todo ello en cumplimiento de los requisitos de la convocatoria el plazo para efectuar las altas en el iae finalizó

estamos a día cinco de junio por lo que actualmente se están analizando las altas remitidas y calculando el segundo pago a efectuar

para personas desempleadas están gozando de las mismas señalar que estas ayudas están relacionadas con el plan de emprendimiento del plan de empleo del gobierno vasco por eso entendemos que sí es importante el requisito de que esas personas sean desempleadas en contra de lo que decía

para terminar el gobierno continúa trabajando para crear las condiciones propicias que fomenten la actividad económica que es la que generara empleo en este caso

y cuyos primeros resultados empiezan a verse aunque todavía de forma incipiente

eta laguntzeko eta alderdi sozialistarena itxaso jauna quizás sea por el error que usted ha reconocido aquí

de su enmienda original no lo entendíamos

desde el inicio sin comprobar el cumplimiento de los requisitos y después si no se cumplían que se devolviera sentitzen dut baina hori guk horrela ezin genuen inolaz onartu

inportantea gobernua jipoitzea denez donde dije digo

y cuando se hablaba de una resolución de dos mil trece de que se cumpliera una resolución de dos mil trece cumplida y abonada como he explicado

en la transaccional se habla de futuro de la convocatoria para este año dos mil catorce una pequeña diferencia pero de gran calado podían también haber aprovechado

por ejemplo o incluso más porque aprovechando que tangencialmente entraba

o también incluso podían haber hablado de resoluciones de la dirección de familia y como también dependen

pues aprovechando el viaje pues haber también establecido otros requisitos para otras resoluciones

iniciativa original pues ya está aprovechamos el viaje y venga venga requisitos para todas las resoluciones

para la legislatura próxima también nos parece la verdad una falta de respeto y rigor absolutos esta forma de proceder

bai eskerrik asko presidente andrea nos decía la señora arregi que claro que está ella de acuerdo con la iniciativa inicial pero usted misma nos ha dicho en esta tribuna

para que no vuelva a suceder en un futuro lo que ha sucedido con estas convocatorias retraso en el pago de las ayudas y de paso subsanar posibles deficiencias que hemos detectado

a la hora de presentar los diferentes plazos tanto por las entidades colaboradoras como por las personas

solicitantes dice que nos quedemos con lo positivo que se ha abonado sí se ha abonado pero tarde estas ayudas

de la sociedad vasca este gobierno tenía que tener este asunto como prioridad absoluta

lujos como retrasos en el pago de estas ayudas porque este tema debería de ser absolutamente prioritario para este gobierno

vamos a los hechos ha habido un retraso en el pago de las ayudas

que hacemos en la enmienda de transacción referencia a que

se aprueben en el actual periodo de sesiones o se proceda a la convocatoria respecto a esas ayudas antes de finalizar

es que no sé cómo ustedes no van a votar a favor de este punto es que no pensaban sacar la convocatoria correspondientes al ejercicio dos mil catorce

está aquí el consejero no pensaban sacarlas yo no sé qué es lo que les molesta de la enmienda de transacción en la que le ponemos

es que estas ayudas que han tenido un retraso correspondientes al dos mil trece no pensaba este gobierno que tuvieran una continuidad cuando hace unos meses no se ha presentado el plan de emprendimiento por cierto con dos años de retraso

el asunto del empleo es una prioridad para este gobierno no nos digan que es una prioridad porque luego cuando vienen convocatorias concretas ustedes tardan en abonarnos y encima cuando les ponemos deberes concretos para que la convocatoria correspondiente al ejercicio dos mil catorce pueda venir la puedan aprobar ustedes dicen es que aprovechamos una enmienda de transacción para ponerlo

pero sería sorprendente que el partido que apoya al gobierno el partido nacionalista vasco votara en contra

claramente por lo tanto yo lamento que este gobierno

se les ha puesto claramente en evidencia resoluciones confusas precipitación plazos cortos se paga cuando se paga

de estas cantidades de estas ayudas no se pueden retrasar

negocios con todos los trámites que eso conlleva con todo el desembolso económico que eso conlleva y esto ha ocasionado perjuicios a ciudadanos concretos por lo tanto señorías

hechos y acciones y no nos vengan con otras historias eskerrik asko garrido andrea zulaika andrea

como he dicho antes de qué criterios habría que cambiar de la resolución o como he comentado ya en mi primera intervención

y vemos que en concreto respecto a este programa o esta resolución

que se tendrían que modificar y entiendo que cuando la señora arregi me ha dicho que el criterio que sea uno de los criterios

que está dentro del plan de empleo

al emprendizaje al emprendimiento que dependen del gobierno vasco creo que se han incluido dentro

ayude a la financiación a la inversión y demás pero por eso entendemos

se les cierre la puerta simplemente eso en cuanto a los criterios y en cuanto

como he explicado creo que la enmienda transada mejora la nuestra sobre todo

instar al gobierno vasco a que publique la convocatoria del dos mil catorce en este periodo de sesiones

tiene que ver con una iniciativa que se ha transformado en su contenido

pero a continuación yo le hago una pregunta si tiene a bien luego responder en su turno

para qué sirve un parlamento señora arregi porque

golpear al gobierno pero qué es golpear al gobierno si nosotros hemos hecho un pacto con ustedes precisamente para auspiciar estas políticas pero eso no es aquiescencia para todo a lo bueno a lo malo a lo mediopensionista es decir

y creo que la del resto que está en la misma línea es controlar e impulsar y lo que aquí estamos acordando no es otra cosa que a los gobiernos no solo a este sino a todos los gobiernos

les sienta mal que la oposición plantee las pautas

a todos seguramente no les hace gracia alguna que sea la oposición

esas dinámicas pero obviamente la oposición tiene que hacer su papel

yo ya sé que al gobierno le gusta que las críticas

pero cuando hay cosas que poner en solfa cuando hay censurar cuando hay que hacer crítica a la acción o a la omisión o a la dilación

nunca va a tener buen tono para quien recepciona el mensaje eso es así pero es que nosotros no podemos dejar de hacer el papel que nos corresponde señora arregi

venimos a decirle ustedes van muy lentos en este capítulo que es muy importante y que ustedes mismos lo proclaman van lentos y eso puede obedecer a cosas ajenas a la voluntad del gobierno sí

y cumplan la finalidad y el destino para el que están previstas por supuesto todas las políticas de empleo pueden ser objeto de opinión de discusión y de análisis y de diferentes interpretaciones

son las que están bueno llévense a cabo de eso es de lo que nosotros hablamos una y otra vez llévense a cabo porque lo que vemos el ritmo que aplica el gobierno a estas políticas que tendrían que tener una prioridad y tener un ritmo realmente en fin de atleta no lo están siendo así no lo están siendo así y eso nos preocupa nos preocupa que se estén demorando tanto las cosas y por ejemplo en la convocatoria de ayudas a los planes locales de empleo

a plantear debido a los retrasos hasta el treinta y uno de mayo del dos mil quince claro ese decalaje entre los presupuestos del dos mil trece y terminar o ejecutar esos planes en dos mil quince supone una espera muy larga o un

que hay que tratar de acortar eso y por eso

sino a decirle qué cosas creemos que pueden ser mejoradas y a aportar

mire señora garrido y esto también vale para usted señor itxaso lo que me molesta es la falta de rigor

ustedes en su iniciativa original hablaban del cumplimiento de una resolución de dos mil trece que estaba cumplida que está cumplida en el momento que se presentó la iniciativa original y cuando la señora proponente se da cuenta de su metedura de pata entonces coge llega a una transaccional y habla de lo que tiene que ser a futuro

absolutamente de todo cómo no señor itxaso y así se hace

lo que no puede ser es que me presenten una iniciativa hablando de una cosa del dos mil trece me podían haber presentado una de mil novecientos veintisiete y ahora resulta que estamos hablando de una de dos mil catorce

eso es lo que no me gusta me parece que no es honesto y que además se está faltando al rigor

la proponente para salir de la metedura de pata de su iniciativa original deja de hablar de las resoluciones del dos mil trece no señora garrido no se enfade porque es así no hay una sola mención

es respecto al dos mil catorce para hacerlo pues eso a futuro

para saber que lo que tenía que haber hecho es si se da cuenta de que eso ya estaba abonado y no quería

decir al gobierno que sí que había cumplido y quiere seguir insistiendo me parece estupendo y ahí está el impulso que dice

lo que tenía que haber hecho es presentar otra iniciativa legislativa

exigiendo o diciendo e intentando acordar con el resto de grupos

han de tener pero no me hable de una cosa y después aquí vaya y acuerde otra totalmente diferente y además incluso

para explicarles que si es que han visto algún inconveniente alguna pega si se pueden mejorar pero hay muchos pasos previos mediante esta forma por lo menos chapucera de meter ahora deberes al gobierno para el año que viene cuando estábamos hablando y usted le hace la justificación de su iniciativa original cuando estamos hablando del dos mil trece y ahora pues eso por arte de birlibirloque pasamos al dos mil catorce y venga

diferentes requisitos que establecen que a su juicio

pues hay varios que son contrarios al procedimiento administrativo establecidos en las convocatorias subvencionales como por ejemplo el tema de flexibilidad de los plazos los plazos deben de estar establecidos

administrativo ni de la oficina de control económico sigo insistiendo ante la metedura de pata inicial pues en vez de retirar la iniciativa pues nada una patada para delante

y hablamos del dos mil catorce y como todo vale pues venga ahí ahora le establecemos al gobierno unos deberes para la convocatoria del dos mil catorce pero insisto en que a nuestro modo de ver todo tiene un límite y la transaccional de hoy es un buen ejemplo de ello aprovechar y meter absolutamente todo con pinzas ya sé ya sé que muchas veces se hace en este parlamento pero yo creo que las cosas tienen un límite y creo que existe muy poco rigor en ese sentido comunicarles que la convocatoria de ayudas para este año está preparada por parte de lanbide para sacar una nueva convocatoria de fomento al emprendizaje que no es porque ustedes hoy hayan venido con esta iniciativa porque le recuerdo que hablaba de dos mil trece

y que está pendiente de los últimos trámites jurídico administrativos y usted señora garrido insistía e insistía en que llevábamos dos años de retraso

porque no estábamos gobernando y le recuerdo por si se le ha olvidado que ustedes los de el partido popular sostenían

sartuta azterketa erregionalen emaitzak ere a pesar de que se han realizado progresos por parte de los diferentes países

siguen persistiendo desafíos para la plena aplicación del programa de acción y para la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio

sobre el acceso universal a la salud sexual y reproductiva

requiere de una legislación adecuada y de políticas y programas que garanticen y promuevan los derechos humanos la dignidad y la igualdad para todas y todos

bi para lo cual promoverá la aplicación de leyes y políticas para respetar y proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y aboga por la aplicación de leyes para proteger a todas las personas contra la discriminación la estigmatización y la violencia